el artículo sesenta y tres del reglamento establece que para iniciar esta sesión plenaria de control

en treinta y ocho por lo tanto habiendo contado a sus señorías y viendo que no hay tal número procede suspender la sesión queda terminada por lo tanto